que obliga a las personas que perciben la renta de garantía de ingresos a ser requeridas para realizar trabajos en beneficio

y la disponibilidad obligatoria para la realización de cualquier tipo de trabajo en beneficio de la comunidad u otras de carácter social dicha disponibilidad obligatoria va en contra del derecho subjetivo de dicha prestación

edo zigor bat ipini behar zaiela eskubide bat gauzatzeagatik entendemos que las prestaciones económicas no tienen que ser entendidas como ayudas sociales

que tiene que estar protegido y garantizado por las administraciones públicas defendemos un modelo de garantía de ingresos y de inclusión no

plena siendo la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda hoy insuficientes un medio y un acicate para ello para la inclusión social la creación de un prestación

servicios a la comunidad se dice para la obtención de un derecho implica la comparación efectiva entre una persona perceptora de un derecho social

por conductas delictivas hay que recordar también que un gran número de estas personas que reciben estas prestaciones son mujeres y familias monoparentales

si todo el dinero público que se vaya a invertir en este tipo de programas se utilice para incrementar los presupuestos para la renta de garantía de ingresos recordar

todavía no se ha recuperado es otro de los recortes que se dieron vía presupuestos seguiremos presentando iniciativas para que miles de personas puedan recuperar lo que se les ha quitado con estos recortes

que reciban garantice de verdad el derecho a vivir

diru sarrera bermatzen die y extrapolando los datos de gipuzkoa al resto de herrialdes el esfuerzo presupuestario necesario rondaría aproximadamente

un incremento que no alcanza siquiera el ocho por ciento del presupuesto destinado el año pasado al sistema de garantía de ingresos cómo no va a ser posible invertir en las personas cuando se dejan sin gastar setenta y seis millónes de euros alguien nos tendrá que explicar

el grupo eh bildu plantea la modificación del artículo seis referido al requisito del empadronamiento modificando el requisito del empadronamiento de tres años a uno y la derogación del artículo nueve que hace una referencia

a ser requeridas para realizar trabajos en beneficio de la comunidad aldaketa horiek eta beste batzuk

como el que estamos viviendo aumenta significativamente

de ayudas sociales y en consecuencia el esfuerzo presupuestario que tienen que hacer las administraciones públicas con una merma

a otras necesidades en este sentido casi la mitad del presupuesto del departamento se destina a financiar las prestaciones que tienen que ver con el sistema de garantía de ingresos

el sistema de protección de euskadi

y de toda europa es uno de los sistemas más solidarios con las personas

desembolso económico mucho mayor que se hace el que se hace en el resto de comunidades autónomas beraz krisialdi garai hauetan

egonkorragoa egiten al mismo tiempo como hemos defendido en reiteradas ocasiones desde el partido popular es necesario vincular el sistema la empleabilidad y la activación para el empleo de las personas receptoras de ayudas sociales

servicio vasco de empleo que asume la tramitación y resolución de las prestaciones económicas renta de garantía de ingresos

de un empleo los datos que hemos manejado también en reiteradas ocasiones nos demuestran que más

pueden llegar a ser empleables el gran reto por tanto señorías es la inclusión laboral

en definitiva que el sistema no solo tenga puerta de entrada sino también puerta de salida con el acuerdo alcanzado la pasada legislatura se introdujeron

aspectos muchos de ellos a instancias del partido popular en la normativa vigente por un lado

de los requisitos de acceso así como la revisión de los requisitos la revisión del cumplimiento

así se estableció el requisito de empadronamiento en tres años o uno de empadronamiento y cinco de vida laboral de actividad laboral remunerada

por otro lado entre las obligaciones entre las nuevas obligaciones entre los preceptores de ayudas sociales

de mantenerse tanto la persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad cuando de forma extraordinaria sea requerido por la administración a través de organizaciones de acción voluntaria

absoluta los menores de veintitrés años y personas también que a juicio de lanbide puedan estar eximidas por diversas circunstancias el derecho a la rgi también se extingue si se rechaza un empleo

se permitía hasta tres veces rechazar un empleo para que se extinguiera el derecho eh bildu berriro bere proposamenarekin

azaldu ditudan gauzengatik compartimos algunas de las ideas que manifestaba la señora

otro discurso la señora consejera

intervenciones lo siguiente la transformación de una política de protección social basada en el empleo y no en el subsidio es el reto más apasionante

en la que estamos inmersos es la activación para el empleo de quienes alejados de él solo tienen un futuro

en el desempleo una cuestión crucial para garantizar por lo tanto es garantizar que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan

como estamos viendo en las cifras que se nos van proporcionando y de las situaciones de necesidad

hay que incrementar también el celo por parte de las administraciones públicas para evitar las posibles situaciones abusivas si las hubiere situaciones abusivas que todos sabemos que existen y ante las cuales no podemos sin duda señorías mirar para otro lado

estamos a favor de mantener el requisito de tres años de empadronamiento o uno y cinco de vida laboral actualmente recogidos en la normativa vigente

en beneficio de la comunidad creemos que dicha previsión se adecua a lo establecido

absolutamente razonable y oportuno parece ser que esta legislatura somos más grupos los que coincidimos en estos aspectos

con el voto del partido socialista de euskadi y el partido popular otros partidos parece ser que han modificado su posición será por aquello de que no es lo mismo ver los toros

en cualquier caso la posición apuntada es la que siempre en coherencia ha defendido el partido popular en este asunto

se ha criticado dicha medida y la posibilidad de que se realice en ese ámbito los trabajos a la comunidad ahí tenemos la posición de ekain redes para la inclusión social que lo ha manifestado clarísimamente

de poder debatir el por qué esa posición es mejor o peor que otras ellos lo han dicho claro no es una medida

realicen ese trabajo en el tercer sector para nada arartekoak ere

no veo ninguna voluntad es evidente de tomar medidas que favorezcan a las personas que se encuentran sin empleo porque el empleo es el objetivo sí pero cada vez tenemos más paro quizá también porque las medidas que estamos tomando para generar empleo no son las adecuadas

en paro y sin ningún tipo de protección social sin ingresos en situación de exclusión o cercana a la exclusión social entendemos que estas medidas se deberían de tomar por todas las personas de todos los grupos políticos que estamos

eh bildu en cualquier caso seguirá trabajando proponiendo iniciativas y peleando con el objetivo de que todas las personas tengan asegurada una vida

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señor lehendakari efectivamente

al empadronamiento bajar de tres años a un año el número de años de empadronamiento exigible es decir corregir la modificación planteada en el año

lado suprimir la obligación de realizar trabajos comunitarios como condición indispensable para acceder a estas ayudas ya en su momento

nos opusimos desde upyd a la modificación de la ley precisamente en estos dos puntos ni compartíamos que se ampliara el tiempo de empadronamiento

de los trabajos en beneficio de la comunidad digamos que las dos obsesiones del partido popular que no le quedó más remedio al entonces lehendakaripatxi lópez que tragar para seguir efectivamente esa modificación legal salió adelante y upyd votó en contra de esas modificaciones consideramos que eran dos modificaciones que eran dos recortes sociales por un lado el tema del empadronamiento

los trabajos en favor de la comunidad algo que es imposible de aplicar y de llevar a la práctica por lo tanto no compartimos

de convertir en sospechosos a los beneficiarios de las ayudas sociales y tampoco la pretensión de algunos que son básicamente los mismos por otro lado

que el fraude social supuestamente existente es algo así como el principal problema que tenemos en euskadi esto es absolutamente falso

se dice efectivamente aquello de las estrecheces presupuestarias para impulsar en aquel momento la modificación

lo que se plantea también por algunos grupos para no corregir aquellas modificaciones legales establecidas en el año dos mil once entendemos que son excusas excusas injustificadas como son excusas injustificadas también

en el criterio del gobierno vasco no podemos hablar no aceptamos que se impulsen nuevos

o que se consoliden los ya existentes mientras se mantiene el gasto superfluo actualmente existente en euskadi y otra vez tenemos que hablar

se niega a corregir y las duplicidades y las ineficiencias que provoca y por lo tanto el gasto superfluo inmenso que provoca o el sector público societario conformado por centenares de empresa públicas

no tienen función social reconocibles o la reticencia

para luchar más y mejor contra el fraude fiscal en eso nos deberíamos centrar para asegurar el bienestar del conjunto de los ciudadanos en lugar de impulsar recortes sociales o consolidarlos se habla decía de estrecheces presupuestarias sin embargo las estrecheces presupuestarias parece que solamente existen para algunos ciudadanos de euskadi

por parte del gobierno vasco a la real sociedad para la modificación de un campo de fútbol cincuenta millónes de euros para san mames barria

arena más de ciento cincuenta millónes de euros para el metro de san sebastián y otros gastos absolutamente superfluos o innecesarios o al menos

los mismos que defienden estas supuestas inversiones son los mismos que lo que hacen es impulsar recortes sociales o

se nos dice que el sistema vasco de protección social es el mejor de españa y es cierto pero es mejor mantenerlo o mejorarlo e impulsar que impulsar recortes sociales los recortes sociales deberían ser por lo tanto el último resquicio la última opción de cualquier

en fin nosotros finalmente nos hemos abstenido ya hemos explicado cuál es nuestra posición histórica mantenemos por lo tanto nuestros argumentos y es por esta razón

nos hemos abstenido es una iniciativa planteada por eh bildu nosotros no podemos votarla porque entendemos que no hay mayor recorte social

del pasado en todo caso ahí están nuestros argumentos y ahí está nuestro voto abstención eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal sozialistak taldeko

el grupo socialistas vascos hemos votado en contra por varias razones que voy a explicar en primer lugar porque la propuesta formulada parte de un supuesto

que la modificación legal del dos mil once de subir el requisito del padrón de un año a tres haya dejado desprotegidos a muchos ciudadanos y especialmente a los inmigrantes voy a recordar lo dicho por el grupo socialistas vascos en el debate de la última reforma de la ley de dos mil once que cuando se pone en el centro del debate el enpadronamiento se parte

a determinados beneficios sociales y los socialistas negamos la mayor quien llega a euskadi desde otras tierras lo hace porque ve una oportunidad de trabajo y una vida mejor todos los datos estadísticos muestran que la inmigración aumentó en la primera década

cuando empezó la crisis empezaron a regresar a sus países o a otros lugares recordar que hasta dos mil ocho se pedían tres años de empadronamiento

y venían más personas inmigrantes a euskadi que cuando se pedía un año de empadronamiento no existe ni un solo dato desde que en dos mil once aprobamos esta modificación que indique que el tiempo de empadronamiento haya sido un factor para impedir la integración social en segundo lugar apuntar que eh bildu plantea esta proposición sin que exista un estudio o un informe que avale esta teoría que legislar de oídas o por suposiciones demagógicas no es una labor seria para este parlamento la renta de garantía de ingresos es un sistema pensado para el conjunto

y como también dijimos en dos mil once tiene requisitos absolutamente opinables y discutibles es opinable y discutible establecer el requisito de veintitrés años para acceder a esta renta y por qué no dieciocho hogei o hogeita bat eh bildu no plantea modificar el requisito de edad

o uno si se acreditan cinco años de vida laboral o también podríamos discutir por qué exigir cinco años consecutivos de empadronamiento para quienes no lleven ni un año en el municipio que es otro requisito que propone eh bildu y qué decir cuando una persona posee aportaciones financieras subordinadas

como patrimonio aunque no puedan disponer del dinero esto tampoco lo contempla eh bildu como modificación hay muchas cuestiones de la ley que son opinables y modificables en tercer lugar y en cuanto a la modificación sobre realizar trabajos comunitarios esto está pendiente de una regulación

no se ha puesto aún en práctica tendremos ese debate en su día en cuarto lugar quiero destacar que en los muchos debates y comparecencias sobre nuestro sistema de protección social

los socialistas hace veinte años comenzamos con un plan de pobreza como un concepto solidario

y hace dos y medio unimos el derecho de tener unos ingresos mínimos con el derecho a la integración social y laboral pretendíamos implantar el sentido de la corresponsabilidad

es porque no quiere trabajar o que la renta mínima es un imán para atraer a quienes solo quieren vivir de los subsidios sabemos que la inmensa mayoría de los perceptores son pensionistas que completan sus pensiones trabajadores en precario o con situaciones familiares complicadas

única fuente de ingresos y de estos últimos solo una parte son inmigrantes

demagógico que liga la inmigración ayudas sociales y mucho menos al fraude como pretende plantear el partido popular los socialistas creemos en una sociedad en la que los ciudadanos y ciudadanas vascas independientemente de su lugar de origen tienen iguales

en el sentido que plantea el grupo proponente sea una cuestión presupuestaria como alega el gobierno

expuesta con anterioridad porque estamos convencidos de que nadie vive solo de recibir ayudas sociales y lo avalan las encuestas y los estudios realizados por el gobierno vasco

de actuación política durante el año y esas las decidimos aquí en este parlamento el grupo nacionalistas vascos cuando estaba en la oposición fue muy crítico con muchas de las modificaciones

que cada cual haga lectura de esto los socialistas vascos podemos compartir que la ley para la garantía de ingresos e inclusión social es revisable pero por razones sociales no presupuestarias y revisable en todos los requisitos que establece la ley como imagino que también lo serán los que ponen la diputación foral de gipuzkoa para acceder a las ayudas y la actual ley puede tener cuestiones a revisar y corregir en su aplicación no en su definición como instrumento completo de integración social y laboral

los socialistas entendemos que la ley que da derecho y oportunidades que ofrece un colchón de seguridad

por el camino pero también que puede suponer una puerta de salida en forma de activación laboral y evitando así que las personas se cronifiquen en el sistema sabemos que el contexto actual de crisis no facilita esta puerta de salida pero nuestro empeño es seguir mejorando la herramienta a nuestro alcance con esta ley y termino

que ha dado sobre el número de personas que cobran la renta de garantía de ingresos que se ha incrementado considerablemente los dos últimos años y que cada mes cobran seiscientos personas más sin embargo en los datos de las personas que quedan fuera por causas de empadronamiento
usted no ha concretado nada se ha alimentado eskerrik asko sarasua andrea

lege aldaketak ekarri zituen neurrien ebaluazioa egiteko eta ez dago txostenik honen inguruan ezta la modificación del artículo seis de la actual ley en vigor rebajando el período de empadronamiento previo de tres a uno año supondría un incremento notable

de otras partidas presupuestarias el departamento de acción social junto a los de salud y educación son los que mayor peso tienen en el presupuesto del gobierno y se han de mantener pero hemos de ser conscientes de la situación

con el gasto y las propuestas que se plantean máxime si suponen contraprestación económica el reconocimiento de derechos y la garantía de nuevas prestaciones de servicios

en estos momentos de crisis económica sostenida creemos imprescindible dar la mayor cobertura posible a los y las que peor lo están pasando para ello

tanto a nivel estatal como internacional la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social es una buena ley aprobada por amplia mayoría de este parlamento en una coyuntura económica muy distinta a la actual como todos ustedes conocen gure ustez inportantea da

por delante de países como los países bajos bélgica y dinamarca tan solo suecia obtiene mejor índice la tasa de riesgo de pobreza en euskadi es veinte coma cuatro la de españa veintisiete y la media europea veinticuatro coma dos

el artículo que se pretende derogar habla de la necesidad de estar disponible para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de forma extraordinaria

a petición de este parlamento realizó un estudio que planteaba algunos ámbitos de actividad en los que se podrían realizar los trabajos en beneficio de la comunidad que de momento no ha sido desarrollado en su totalidad los trabajos en beneficio de la comunidad los contemplamos como una forma de mejorar

en ningún caso como una contraprestación siempre hemos mantenido que dichas labores a favor de la comunidad extraordinaria y en ningún caso pueden realizarse en detrimento del trabajo remunerado

las contemplamos como contrapartida sino como una forma de mejorar la empleabilidad y socialización no habiendo sido desarrollado en su totalidad este artículo

en contra de la modificación puntual de los dos artículos de la ley lo cual no significa que el gobierno vasco y el grupo que lo sustenta no estén trabajando todos los días por mantener el sistema de protección social que tenemos askotan esan dugunez

doa traemos hoy a esta cámara una iniciativa con un planteamiento humilde pero que complementa y acompaña

más complejos y ambiciosos que tiene esta cámara en los próximos tiempos definir qué país queremos y cómo lo vamos a estructurar para los próximos treinta años para ello tenemos la ponencia como primer estadio es este un asunto del que se venía hablando desde hacía

lo repetimos a menudo euskadi es un país pequeño con tres niveles institucionales cuatro si contamos al gobierno central y cinco si sumamos también a la unión europea

en solitario el gobierno vasco sino que también deben comprometerse en esta tarea y acompañarle las diputaciones forales y los ayuntamientos caímos en la trampa

le correspondía ofrecer todos los servicios y prestaciones al ciudadano sin importarle si eran de su competencia sin mirar si ya lo hacía la administración de al lado

y eficiente y sobre todo para servir mejor a los ciudadanos que a fin de cuentas es el propósito y el objetivo de esta proposición una proposición que no surge de la nada

que los socialistas vascos hemos puesto en impulsar este debate sobre la necesaria reforma de las administraciones públicas para traer al siglo veintiuno nuestro entramado institucional vasco fuimos los socialistas vascos los que sacamos este debate a la opinión pública durante la legislatura pasada fue el gobierno socialista durante la legislatura pasada quien inició el camino de reducir el sector público de la comunidad autónoma vasca especialmente

así como en el sector de la agricultura y pesca y en las empresas participadas

del gobierno realizamos el informe de duplicidades e ineficiencias de las administraciones públicas vascas primer intento serio de detectar y documentar los derroches y gastos superfluos en los que incurren nuestras administraciones en ocasiones

en la que comparecieron reconocidos expertos y que sirvió como primer diagnóstico de este problema y hemos sido los socialistas vascos los que de forma

venimos reclamando desde hace años la actualización y modificación de la ley de territorios históricos para modernizar el país y clarificar las competencias

este panorama competencial que ha venido también a complicarse mucho desde la aprobación de la ley de sostenibilidad y racionalización del gobierno del partido popular

firmamos un acuerdo con el pnv y con el gobierno vasco que tenía como uno de sus cuatro pilares la revisión de la arquitectura institucional vasca y la reforma de la administración para hacerla más competitiva más eficiente y más sostenible un acuerdo que desgranaba una serie de iniciativas que ambos partidos nos comprometíamos a llevar acabo

fruto de ese acuerdo nace esta iniciativa que hoy debatimos aquí en esta cámara y que está siendo debatida también en las juntas generales de los distintos territorios

en trabajos concretos planes informes y en leyes que nos permitan depurar las deficiencias de nuestra arquitectura institucional y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía vasca

el rendimiento dando respuesta a los problemas que van surgiendo y puliendo los defectos que vayan poniéndose de relieve en esta tarea euskadi

de nuestro sistema de autogobierno somos tres territorios pero un solo país y no debemos perder esa visión de conjunto por eso el papel de este parlamento

que hoy traemos a colación pero como decía tenemos que ir paso a paso hoy venimos con una propuesta de base que habla del necesario diálogo entre las administraciones

los ayuntamientos y el gobierno vasco para identificar aquellas áreas en las que puedan encontrarse duplicidades e ineficiencias eta hurrengo astean bide honetan

al contrario como habrán comprobado en los dos puntos que hoy sometemos a debate reina más la apelación al diálogo y al entendimiento que a las exigencias inasumibles

al que aspira cada una de las formaciones presentes en esta cámara se abre un amplio terreno de juego sobre el que caminar dialogar y acordar

pero es necesario que hoy también apelemos al diálogo interinstitucional y al compromiso

y el papel del parlamento vasco como centro de la política de este país por lo tanto apelamos

y sin tabúes a abordar ese debate en la ponencia y ha defender el papel del parlamento vasco como órgano que tenga la visión del país completo yo confío en que el resto sepan ver esta oportunidad a pesar de que parece que muchos de los grupos salvo los proponentes no van a querer entrar en el consenso de esta proposición no de ley pero esperamos que el camino en el recorrido que tenga
y su posterior dictamen podamos encontrar acuerdos que en definitiva sirvan para los ciudadanos vascos que es a quienes servimos nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

nork garatu ditzakeen eskumenak hoberen eta merkeen a través de esta iniciativa instamos a las diputaciones forales y al ejecutivo vasco

con el objetivo de acabar con estas situaciones teniendo como objetivo la clarificación competencial y la eficacia en la gestión

a través de un procedimiento de garantía jurídica les emplazamos a valorar la posibilidad de que sociedades públicas actuantes en sectores equivalentes

con todo el respeto eso sí a la legalidad y a la potestad de autoorganización que se reconoce a cada una de las instituciones en esta vida todo incluso lo que está bien hecho es mejorable y me van a permitir que comparta con ustedes una anécdota de mi adolescencia recuerdo que cuando nos daban las notas y yo iba contenta a casa a decir que había sacado un nueve

entonces reconozco que me solía enfadar bastante pero

precisamente de eso se trata se trata de mejorar lo que tenemos decía en euskera que el sistema

ha dado sus frutos y que el balance de estos treinta años

los diferentes indicadores de desarrollo que tenemos en euskadi así lo avalan quiere decir que en algunos casos no hayamos tenido problemas de ajustes quiere decir que todas las competencias estén bien definidas

entre los distintos niveles institucionales que operan en euskadi evidentemente hay que perfeccionar eso es así treinta años no pasan en balde tenemos nuevos retos nuevas coyunturas

para revisar nuestro entramado con el objetivo de mejorarlo entre todos tenemos que definir

se deberá vertebrar la euskadi del futuro seguramente la revisión del sistema pueda implicar que haya que modificar distintas leyes no solo la ley de territorios históricos si alguien está pensando en esto habrá que hacer las modificaciones que haya que hacer pero lo tendremos que hacer

la justificación de la iniciativa tal y como lo ha señalado ya la señora mendia se relatan los pasos que venimos dando en relación con la puesta a punto en nuestro sistema se hace referencia al informe sobre duplicidades

se hace también referencia a las distintas comparecencias que se sustanciaran en este parlamento y recordamos también que en la presente legislatura se ha constituido una nueva ponencia

de las competencias de las administraciones que actúan en nuestra comunidad y precisamente como ya se ha mencionado el próximo viernes tendremos la ocasión de analizar

y en la parte dispositiva de nuestra iniciativa instamos al gobierno vasco y a las diputaciones forales a iniciar ese trabajo en común

es fundamental además disponer de una foto fija del mapa del sector público de cada una de nuestras administraciones

además todos conocemos la estrategia de racionalización y redimensionamiento de nuestra administración

una reducción del veintidós por ciento de las estructuras organizativas y la estrategia supone también una reducción del veinte por ciento de las estructuras directivas recordar también como lo hemos hecho en alguna otra ocasión que la diputación foral de bizkaia hizo lo propio a inicios de la presente

sería interesante que cada uno de los niveles institucionales realice estudios para que podamos conocer cuál es el mapa de nuestro sector público para vislumbrar solapamientos y proceder a su racionalización

con el grupo socialistas vascos es un paso más en el firme compromiso del pnv

para revisar y simplificar las estructuras organizativas del gobierno vasco y de la administración general y sus entes instrumentales

conformó el gobierno más reducido de la historia de euskadi y además disminuyó en un veinte por ciento los altos cargos y el personal eventual

mendia el resto de los grupos no han querido firmar la enmienda transaccional que les habíamos ofrecido pero tal y como ha señalado la señora

en la correspondiente ponencia para intentar aunar las voluntades de todos los grupos besterik gabe eta eskerrik asko eskerrik asko

agencia estatal de meteorología eta bestetik euskalmet por cierto

nahikoa delako agencia española de protección de datos

sí gracias presidenta el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

relacionada con el entramado institucional vasco y con el sector público societario y nos proponen dialogar colaborar preparar nuevos informes poner en marcha nuevas ponencias realizar nuevas reflexiones

y la posibilidad de a partir de ahí en un futuro más o menos cercano impulsar determinadas reformas legales decía

una oportunidad esta iniciativa no es ninguna oportunidad esta iniciativa planteada por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista de euskadi

dejar todo como está es un timo monumental es una iniciativa falsa fraudulenta y engañosa es pura publicidad y propaganda para seguir mareando la perdiz y no tomar las decisiones

el objetivo fundamental del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi es que nada cambie en euskadi y que todo siga

no quieren acabar con las duplicidades no quieren acabar con las ineficiencias no quieren reducir el sector público societario ineficaz e improductivo nada de esto quieren hacer quieren engañarnos al resto

a los ciudadanos quieren hacer como que hacen pero sin hacer nada es una gran mentira y un timo monumental necesitamos

ni mas estudios nuevas reflexiones nuevos debates nuevas comisiones o nuevas ponencias necesitamos reformar

necesitamos aprobar cuanto antes una ley municipal necesitamos

internamente necesitamos justo lo que los partidos foralistas y conservadores no quieren hacer ellos quieren dejar todo como está seguir manteniendo el status quo seguir repartiéndose el poder

para modernizarnos internamente por eso digo que la iniciativa es un timo monumental un timo absoluto que quiere engañar al resto de partido políticos algunos están prestos incluso

a convertirse en foralista y al partido popular que obviamente está encantado porque sabe que esta iniciativa lo que va a tener como consecuencia dejar todo como está esto es en lo que se ha convertido el partido socialista de euskadi defensor a ultranza del modelo

de la mano del partido nacionalista vasco es un sarcasmo que la iniciativa firmada por el partido socialista de euskadi y por el partido nacionalista vasco califique el estudio realizado la pasada legislatura por el gobierno de lópez como un informe relevante

inaceptable ese informe que ahora llaman relevante

durante la pasada legislatura en cada una de las reuniones de la ponencia de duplicidades

criticar de manera contundente porque decía

y que era una falsedad mayúscula y ahora resulta que llaman informe relevante a ese informe que efectivamente está guardado en un cajón para nosotros sí que era un informe relevante y para nosotros sí que fueron relevantes los trabajos realizados en la pasada ponencia y ya hemos reflexionado suficiente ya sabemos lo que hay que hacer hay que reformar las leyes vigentes para modernizarnos internamente el partido nacionalista vasco

no quieren hacerlo por eso digo que esta iniciativa es una gigantesca nada les impide presentar esta iniciativa conjunta porque carecen de pudor y de vergüenza en el fondo es lógico porque al fin y al cabo más allá de los discursos tanto unos como otros se han negado a mover un dedo para reformar el entramado institucional vasco

la lth o reducir drásticamente el sector público societario ahí están los hechos cuando han gobernado unos u otros no han

estos cambios al revés han dicho que no había que impulsar esas reformas la pasada legislatura en varias ocasiones trajo a debate este asunto upyd la propia reforma de la ley de territorios históricos y el señor

dijo que no se podía empezar la casa por el tejado pues bien ahora se convierten en defensores a ultranza

de ese modelo foral que este gobierno nos pretenda tratar de vender que quiere redimensionar el sector público societario o en fin

al gobierno es una especia de tomadura de pelo es imposible

enfrente la tarea de redimensionar el sector público societario porque dijo hace unos pocos meses que el sector público societario de euskadi no está redimensionado

cómo va a impulsar el redimensionamiento del sector público societario un gobierno que dice que el sector público no está redimensionado

gran mentira parecido ocurre en el caso del grupo socialista no hizo absolutamente cuando estuvo en el gobierno ahí está la historia ahí están nuestras preguntas en relación la pasada legislatura en relación a la ley de territorios históricos

a empezar la casa por el tejado tal como dijo el señor lópez la interpelación la lth registrada y debatida en esta cámara traída por upyd la moción consecuencia de aquella interpelación la solicitud del estudio al gobierno

las ineficiencias y las duplicidades existentes en euskadi ahí están los trabajos de la ponencia de duplicidades y todo lo que pudimos debatir en esa ponencia ahí está la ponencia aunque apagada

dos reuniones en más de un año porque ni unos ni otros quieren cambiar nada ahora se nos trae un nuevo estudio y ahora se nos dice que hay que volver a reunirse

para seguir analizando estudios para seguir analizando informes para seguir escuchando nuevos comparecientes para seguir haciendo nuevas reflexiones para seguir en definitiva

porque el objetivo es claro dejar todo como está y que nada cambie parecido en relación al sector público societario ahí están nuestras preguntas ahí están nuestras solicitudes de información documentada nuestras interpelaciones

nuestras proposiciones no de ley iniciativas que pedían al gobierno el redimensionamiento del sector público societario resultado cinco años después o veinticinco si ustedes prefieren cero está todo como está y ustedes están encantados de que todo siga como está zer da

azkenean herritarrei zerbitzu publiko hobeak emateko hau da gure helburua esto es lo que defendemos por lo tanto en nuestra enmienda

a los ciudadanos y vamos a hacer lo que se debería hacer reformar la ley de territorios históricos aprobar cuanto antes una ley municipal

modificar el propio entramado institucional reducir drásticamente el sector público societario esto es lo que debe hacerse en lugar de plantear

todo como está y nuestra propuesta ahí planteada es una propuesta de mínimos porque habría que ir más allá habría que suprimir las diputaciones forales alcanzar una nueva distribución de competencias más razonable y eficiente entre europa

y ayuntamientos aprobar cuanto antes una ley municipal y fusionar municipios diputazioak eliminatu udal txikienak bat egin

gogor murriztu hau guztia egin beharko genuke por lo tanto hay que pasar de las palabras a los hechos dejar de marear la perdiz
y dejar de engañar a los ciudadanos nada más gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos bien la verdad es que

y ya estaba dudando en si salir o no salir porque claro teniendo en cuenta que el señor maneiro en ese hablar por todos también ha hablado

y lo que vamos a hacer pues una ya dudaba si salir

bien como han dicho otros y como pone de manifiesto la iniciativa el abordaje de las duplicidades y la necesidad de la racionalización de la administración no es algo nuevo

señora mendia viene de legislaturas anteriores y ha sido objeto de distintos informes es una diputación gobernada por el partido popular de las primeras en abordar este tema

cumpliendo el encargo de la diputación foral de álava realizó un informe sobre evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre los tres territorios históricos y el gobierno vasco

en la legislatura pasada y fruto del acuerdo con el partido socialista uno de los puntos una de las prioridades para este grupo fue la posibilidad de que esa necesaria

fuera uno de los puntos claves el contexto económico también creemos que ayudó y que puede ayudar en este momento dadas las necesidades y la presión de la propia sociedad

la iniciativa en la legislatura anterior el gobierno vasco presentó el informe sobre duplicidades e ineficiencias en las administraciones públicas vascas y tomando como punto de partida ese informe se llevó a cabo un profuso trabajo en esta cámara en el que

para dar sus argumentos en relación con nuestro entramado institucional y las duplicidades que pudieran dar lugar el mismo trabajo que quedó inconcluso por la disolución del parlamento y en esta legislatura se ha vuelto a constituir una nueva ponencia y paralelamente

dos informes la estrategia para el redimensionamiento y racionalización del sector público de la comunidad autónoma de euskadi y el informe sobre análisis y funcionamiento institucional en la comunidad

desde el grupo popular queremos poner de manifiesto que el entramado institucional vasco con base en nuestra constitución en nuestro estatuto es complejo claro que es complejo nadie niega esa complejidad y de esa complejidad lo que se deriva es un objetivo que consideramos que debe ser prioritario garantizar su racionalización y la optimización del gasto así como una equitativa distribución de los recursos públicos en aras a lo que yo creo que es un proyecto de todos los grupos

administraciones al servicio de los ciudadanos es difícil llevar a cabo esa coordinación desde luego pero no imposible y yo creo que en eso sí estamos de acuerdo prácticamente todos

la necesidad de que se identificasen las duplicidades las concurrencias para después actuar siempre con criterios de austeridad eficiencia y eficacia como decía no es algo de la legislatura anterior ya les recordaba yo hablando de este tema

en numerosas ocasiones había demandado esto del gobierno vasco de ese momento

y que ponga a la ciudadanía en el centro de la actuación pública como hemos dicho en muchas ocasiones si siempre es preciso actuar con criterios de austeridad eficacia y eficiencia

esta obligación es más imperiosa aún en primer lugar y también se ha hecho referencia aquí es preciso aligerar esa macroadministración que se ha creado

este grupo lo comparte pero lo que no comparte es el instrumento que se está utilizando porque lo plasmado por el gobierno vasco en ese documento se queda corto

y no se trata como dijo el señor erkoreka en su comparecencia de desmantelar el sector público en absoluto pero sí de ir más allá de lo que se plantea en ese documento

cronograma propuesto dilata en el tiempo muchas de las acciones

superan esta legislatura en ese documento la verdad es que las reducciones no son excesivas y tampoco lo realizado hasta ahora y así de los cuarenta y siete puestos directivos que se prevé desaparecer solamente se habían reducido en quince en otras administraciones también tienen sus planes

así por poner un ejemplo en la diputación foral de álava la reducción de altos cargos y de cargos de confianza ha sido superior al veinticinco por ciento las empresas públicas ya se han

en cuatro por lo cual esa instancia a que se reduzcan las empresas públicas hay en algunas diputaciones que no tiene sentido no sabemos

yo creo que en eso estoy de acuerdo con el señor maneiro creo que de lo poco en lo que estoy de acuerdo es que

obras son amores y no basta reflejarlo en documentos es necesario que se realice y luego tenemos el otro informe el informe sobre análisis y funcionamiento institucional de la comunidad autónoma de euskadi que es el que ha servido de base a la ponencia que iniciará sus trabajos la semana siguiente este informe además se ha presentado sin esperar a las alegaciones de dos de las diputaciones y en esa carrera por la anticipación es donde nosotros encuadramos esta iniciativa que llega antes incluso de la presentación formal del informe que como digo tendrá lugar en esta cámara la semana que viene de la lectura de ese informe se saca que hay que establecer una previa y dos conclusiones la previa

que es relevante el realizado en el gobierno anterior de una lectura más profusa del mismo lo que hace es desacreditarlo y además no contienen ninguna valoración económica

modificar la arquitectura institucional del país vasco compartimos esa arquitectura lo cual no quiere decir que la distribución competencial y lo que es más importante la distribución de los fondos públicos entre los distintos escalones competenciales no pudiera ser mejorada como decía la representante del pnv para conseguir ese diez sin embargo esa

aborda más allá de la necesaria colaboración y coordinación entre y la segunda conclusión a la que se puede llegar es que las responsabilidades de las duplicidades y las ineficiencias recaen en el estado en lo que ya es una obsesión del partido nacionalista vasco compartida codo con codo con bildu son las competencias no transferidas la no culminación del estatuto

por ello una de las recomendaciones es adecuar los servicios del gobierno central en euskadi y concretamente en lo que ya si lo otro es una obsesión esto ya raya la obsesión más absoluta es la desaparición el repliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como decía este informe se presentará en la cámara el próximo cuatro de abril y sin esperar

sino tan siquiera a que formalmente el mismo se presente ustedes los socialistas y los nacionalistas presentan esta iniciativa en la que instan a que en función de las conclusiones las otras instituciones realizan sus propios informes choca mucho en función de las conclusiones cuando todavía no es que no pueda haber conclusiones es que no hemos

por lo tanto ustedes no creen que hubiera sido más razonable esperar a las conclusiones creen que es necesario instar a ese proceso de diálogo y colaboración al resto de las instituciones creen que otras instituciones como diputaciones o ayuntamientos no han dado muestras como las comparecencias que se llevaron a cabo en la anterior legislatura en esta cámara que su disposición

es total y absoluta creemos que esta iniciativa además de denotar

parece contener dosis de sospechas hacia otras instituciones como si estas necesitasen una instancia desde este parlamento para llevar a cabo una tarea que ellas mismas consideran imprescindibles a tenor como decía de lo puesto de manifiesto en esta cámara o de lo realizado en otras administraciones en post a la racionalización y redimensionamiento de la misma además

yo no voy a ser tan duro como el señor maneiro al calificar la iniciativa pero sí les diré que no deja de ser un brindis al sol una iniciativa que no sabemos muy bien

y que no sabemos tampoco cuál es su objeto dejemos

establezcamos después entre todos si las competencias están bien deslindadas

y establecer el reparto de los recursos públicos adecuados a dicha asignación

de todos los grupos políticos que es el rentabilizar el gasto público y ganar en capacidad de servicio a los ciudadanos en eso estamos todos sin pausa pero sin prisas

bien yo creo que aquí por una parte no se ha entendido o no se ha querido entender la razón de la iniciativa

temporal de la misma y ya lo he explicado al principio aquí hay una primera secuencia que se produce al inicio de esta legislatura

y que se constituya una ponencia la ponencia se constituye la ponencia a día de hoy todavía no ha tenido más que una reunión

va a empezar formalmente sus trabajos el próximo viernes con la comparecencia del gobierno para presentar su informe que es verdad que le faltan

pero bien es cierto que las alegaciones de la diputación que han llegado al gobierno tampoco han sido tenidas en consideración a la hora de elaborar el informe luego el informe es absolutamente de parte del gobierno y las alegaciones de las diputaciones pueden ser incorporadas que tampoco nos van a decir ninguna novedad porque como muy bien decía la señora llanos ha habido abundancia de comparecientes en la legislatura pasada y seguramente las tesis serán las mismas y en cualquier caso además

pertenecen a los grupos políticos que gobiernan esas diputaciones con lo cual estarán en perfecta sintonía con esas posiciones ese es el escenario a mí no me parece en absoluto prematura esta iniciativa que evidentemente traemos el partido nacionalista vasco y el partido socialista

como desarrollo del acuerdo que firmamos ambos partidos y entiendo legítimo que el resto de partidos no se hayan querido sumar pero no por eso es prematura porque lo que hace el parlamento es marcar

diciéndoles que tienen que colaborar y que es justo que colaboren y que se coordinen en función de las conclusiones que vayamos alcanzando en esa ponencia y para eso se le requiere a las diputaciones y a los ayuntamientos

con el gobierno vasco y es un mandato de este parlamento por lo tanto a mí no me parece ni extemporáneo ni inoportuno en absoluto y luego

requiere si se quiere abordar con seriedad de estudios de viabilidad porque decía el señor de upyd esta proposición es un timo a usted desde luego le encantan estas palabras grandilocuentes y un poco faltonas no es un timo bueno yo creo que su actitud es un timo a este parlamento y es un timo

porque si se quiere abordar la tarea legislativa con un mínimo de rigor porque aquí a veces cuando los parlamentarios hacen enmiendas

y por lo tanto haríamos mejor en tomarnos seriamente la tarea legislativa que es la principal de este gobierno junto con la del control al ejecutivo por lo tanto para

creo que vamos a abordar varias la ley municipal pero para abordar la ley municipal previamente lógicamente hay que hacer una serie de informes que los está haciendo el gobierno

cómo encaja esa ley municipal con una modificación actualización de la lth a la que no se puede aterrizar simplemente con unas opiniones tendrá que estar fundada en unos informes

que evalúen las competencias que evalúen las duplicidades y que las señalen y que entonces veamos cuál es la mejor manera de evitarlas y eso puede venir de la mano de modificaciones legislativas o de otro tipo de medidas pero evidentemente eso hay que hacerlo con informes por lo tanto está muy bien su discurso señor maneiro pero a mí me parece absolutamente poco serio de cada a la galería que está muy bien a usted le servirá

realmente para arreglar los problemas que tiene este país y además hay que hacerlo todo de acuerdo a la legalidad por lo menos eso es lo que opina el partido socialista y en cuanto a la señora

el debate en un campo que excede de la competencia de este parlamento y que además no es del objeto de la ponencia de duplicidades ni de la tarea que está enmarcada

lo que usted comenta puede ser objeto de debate en la ponencia de autogobierno que hoy se ha constituido en este parlamento puede ser objeto de debate y yo eso se lo admito porque los socialistas también abogamos por un cambio de la constitución y por lo tanto al cambiar la constitución cambias la lista de competencias estatales competencias autonómicas etcétera etcétera y ahí podríamos entrar

básicas del estado y cuáles pueden ser de las comunidades autónomas pero desde luego en absoluto en absoluto

que en un tema que es estrictamente del campo autonómico del campo de las competencias de este parlamento de las juntas generales y de los ayuntamientos vayamos a abordar

aparentemente se duplican entre el estado y la comunidad autónoma y usted sabe que el gobierno socialista ya intentó arreglar con el gobierno del partido popular

de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la comunidad autónoma

yo creo que espero que su posicionamiento de hoy de no votar esta proposición no de ley no impida que ustedes trabajen

sino de llegar para arreglar el país en la ponencia de duplicidades y en las futuras modificaciones legislativas que tienen que estar en esta cámara en los próximos meses como serán la ley municipal o la actualización de la ley de territorios históricos

amaitzera noa lo demás sería engañarnos y hacernos trampas en el solitario

la constitución hay que cambiarla el estatuto

las normativas europeas se pueden cambiar pero cuando entramos en el núcleo intangible de la foralidad en la lth eso es inmutable es intocable

y meterse con lo más sagrado fin de la cita quien dijo esto señora mendia el que se sienta ahí abajo a su derecha en campaña electoral

todo se puede cambiar aquí lo dijo aquí lo dijo todo se puede cambiar y nosotros estamos de acuerdo

queremos cambiarlo las normativas europeas que sean necesarias y la ley de territorios históricos

también sí eso es lo que proponemos voten entonces nuestra enmienda porque los objetivos que planteamos para la reforma

son básicamente los mismos objetivos que ustedes tienen por escrito en su programa electoral que la legislatura pasada por cierto era programa de gobierno

reformar la lth sin temor ni temblor sin miedo no solamente decirlo en campaña electoral decirlo en algún momento específico no defenderlo aquí por la vía de los hechos ya hemos reflexionado

las posiciones están fijadas sabemos todos qué es lo que pensamos sabemos que en esa ponencia vamos a entrar pensando una cosa y saldremos cosa parecida qué es lo que queremos para euskadi lo tenemos todos claro se trata al menos en nuestro caso de decir ya hemos reflexionado bastante llevamos con este asunto treinta años ya hemos aprobado en los últimos cinco años no sé cuantas pnls iniciativas varias sobre este asunto

ya hemos hecho ese trabajo ya sabemos qué es lo que pensamos al menos desde el punto de vista de upyd lo que décimos es nuestra opción es esta esta es nuestra opción es en esto en lo que creemos sabemos que el partido popular no el partido popular es

foralista es peligrosamente foralista incluso y el partido nacionalista vasco quiere mantener todo como está mantener sus ámbitos de poder y que el sector público societario siga como está sin reducirse

eso es lo que ustedes pretenden llevan ustedes año y medio diciendo que el gobierno vasco redujo no sé cuantos altos cargos que sí que sí que ya lo sabemos que lo hizo el primer mes

societario profundamente porque hay centenares centenares de empresas públicas de entes sí han bajado siete menos hay siete menos

cuatro años si se quiere ese es el trabajo que hay que hacer ustedes plantean nuevos informes nuevas reflexiones nuevas filosofadas nuevas ponencias seguir aprobando iniciativas que todavía algún grupo dice que es prematura cuando esta iniciativa es más vieja que la pana es antiquísima

pero ya no vamos a pasar de las palabras a los hechos dejen ustedes sus informes tranquilos

ya tenemos bastantes ya sabemos cada uno qué es lo que queremos hacer ustedes quieren que todo siga igual aquellos ya no digamos estos parece que efectivamente defienden que todo siga igual pero disimulando y tal haciendo como que hacen y estos no sabemos si son foralistas o medio pensionistas o qué es exactamente lo que son

uno de los muchos problemas que tiene esa coalición y sí que se haga con rigor claro que sí con rigor por supuesto con seriedad

llevamos treinta años con este asunto las tesis son las mismas estamos

y sí se presentó ese plan y estrategia del gobierno vasco el veinte de noviembre del año dos mil trece sí y sabemos cuáles fueron las reacciones de todos los partidos políticos incluido el partido socialista que era un cuento chino que era publicidad y propaganda todos los partidos políticos lo criticaron desde el señor damborenea que hizo unas declaraciones sí hasta aquellos y upyd

y ahora resulta que hay que hacer un nuevo informe analizarlo para saber exactamente qué es lo que hay que hacer bueno ustedes sabrán qué es lo que ustedes defienden a nosotros esto nos parece un timo dicho con todo el respeto un timo porque no supone ningún avance y nosotros creemos que hay que hacer lo que

reformar la lth aprobar una ley municipal cuanto antes reducir drásticamente el sector público societario cambiar el sistema sí queremos cambiar el sistema el modelo institucional vasco queremos cambiarlo radicalmente en el sentido de ir a la raíz de los problemas esto es lo que nosotros queremos hacerlo nosotros queremos hacerlo
y ustedes no uno versus setenta y cuatro otra vez gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta bien la verdad es que el debate de este tema hubiera podido durar solamente quince minutos los diez de su primera intervención y los cinco de la segunda señor maneiro porque como usted ha hablado por todos

todos pues con quince minutos ya le digo hubiera sido suficiente usted dice que nosotros no queremos que nada cambie déjeme que diga yo

dónde está lo peligroso en ser foralistas extrema peligrosidad que tiene el ser foralista

en otra ocasión usted me lo explica y además somos foralistas porque somos constitucionalistas o sea la constitución reconoce los derechos históricos con lo cual evidentemente nosotros también somos foralistas pero en cualquier caso pero usted señor maneiro no quiere modificar el entramado usted

dígalo directamente quiere derogarla porque lo que no quiere es que haya territorios históricos luego no diga hay que modificar la ley de territorios históricos no hay que derogar la ley de territorios históricos

hace perdona que se lo diga que el partido nacionalista vasco y el nacionalismo

haciendo una campaña de marketing conseguirían la publicidad que usted les da

hace que el partido nacionalista vasco se frote las manos día sí y día también

campaña publicitaria del partido nacionalista vasco y del nacionalismo vasco con su

no compartimos somos foralistas y somos autonomistas

la ley de territorios históricos pero no para que desaparezcan los territorios históricos sino precisamente para que desaparezcan las duplicidades para que y eso es cierto hubo

daba más servicios a veces que no eran de su propia competencia implicando recursos públicos que cuando ha venido la crisis ha hecho que todos nos tengamos que plantear que existen duplicidades

pero sí y me reitero esta iniciativa es empezar la casa por el tejado

gran parte de las preocupaciones con más vértigo o menos vértigo el partido nacionalista vasco las comparte totalmente porque si uno se va al informe que nos presentará la semana que viene pero que ya podíamos casi obviar la presentación porque estamos todos hablando

cuatro se refieren a la administración del estado en esa ponencia hay distintas ponencias aquí en esa ponencia

una gran predisposición a debatir lo que quiere en cada punto

a hablar de lo que yo quiero pero hombre yo sí rogaría que en esa ponencia de duplicidades habláramos de las duplicidades y del entramado institucional vasco luego hay otra ponencia

entre el estado y euskadi y ya le digo no se preocupe que esa obsesión es compartida por el partido

pero es verdad que parte de las conclusiones de ese informe no las compartimos de entrada ya

incluso la estrategia de redimensionamiento también nosotros compartimos que hay

pero lo que nos parece es que es muy poco ambicioso y que otros han demostrado con hechos una mayor apuesta por esa redimensionamiento que es como se demuestran las cosas el camino se hace andando y es verdad que documentos y el papel lo aguanta todo lo que juzgan los ciudadanos no son los documentos sino que son los hechos

la publicidad que se quiera dar cada grupo nosotros lo compartimos la señora mendia decía que era fruto de ese acuerdo

pero eso no deja de parecernos a nosotros como le decía poner al carro delante de los bueyes

la propia ponencia en la que vamos a debatir en la que van a comparecer todas las instituciones ya estemos diciendo a las instituciones lo que tienen que hacer hombre eso es muy propio del señor maneiro pero creo que

es verdad que hay informes pero lo que es también verdad es que no se llegó a ninguna conclusión y las conclusiones tienen que hacerse entre todos los grupos en el que todos aportaremos

nuestra opinión opinión que vuelvo a reiterar es que es necesario una racionalización de la administración

un adelgazamiento de la administración es necesario hacer una distribución competencial acorde con

modificarla porque en cualquier caso lo que es necesario es que estamos hablando de competencias que implican gasto público que es gasto de los ciudadanos
y que su eficiencia y su eficacia es responsabilidad de todos nada más muchas gracias eskerrik asko

señor lehendakari señoras y señores parlamentarios

nosotros en esta moción tratábamos de hacer lo siguiente

en sanidad de la legislatura pasada y ese fue el planteamiento de la interpelación que formulamos en el pasado pleno al señor darpón de sesiones parlamentarias como la que tuvimos ayer en la comisión de salud o lo que tendremos la semana que viene en el pleno sobre el plan de salud dos mil catorce dos mil veinte pues yo creo que es un momento oportuno para hablar de la cuestión que la moción plantea

concretándolo en el buen gobierno de la sanidad pública vasca y en la participación de sus profesionales algo esencialmente necesario y bien planteado en iniciativas que como las recomendaciones ahí están era necesario es necesario un pronunciamiento de esta cámara sobre esas bases de actuación profesional y de gestión

osasuna zainduz hasta hoy han pasado más de veinte años en aquel debate de veinte de junio de mil novecientos noventa y tres los grupos parlamentarios presentaron una serie de resoluciones de propuestas de resolución que conectan perfectamente

de buen gobierno que se han hecho recientemente y que ahora tratamos de reiterar y de renovar permanentemente

debate sobre las líneas estratégicas de la sanidad vasca el plan osasuna zainduz

el partido socialista el partido popular eusko alkartasuna

unas propuestas conjuntas de actuación en relación con estas cuestiones que entroncan perfectamente con la máxima del buen gobierno de la sanidad y vuelvo a decir hace casi veintiuno años

en el logro de las políticas sanitarias cuestiones que tienen que ver con el desarrollo integración efectiva de los profesionales sanitarios en el servicio público como una visión interna fundamental de la organización

de reconocimiento social para el personal al servicio de las instituciones sanitarias

con que se optimicen los resultados en salud y satisfacción de los usuarios así como los resultados económicos de la actividad sanitaria se desarrollen instrumentos de valoración auditoria y control que garanticen la gestión responsable de los intereses públicos se complete

transparencia libre concurrencia de la contratación de personas bienes y servicios es decir estamos hablando de una serie de cuestiones que tienen que

formación en la gestión la conveniencia de completar

empresarial es decir de estas cuestiones estábamos hablando hace veintiuno años también en este parlamento de una manera estratégica nosotros en ese sentido planteamos esa interpelación en el pasado pleno de control

nuestra iniciativa el veinticuatro de abril ha pasado un año pero

pero vemos que podemos seguir perfectamente avanzando en esas cuestiones además

en este parlamento las recomendaciones eso que se llama el código del buen gobierno redactado por el consejo asesor

asesor de buen gobierno creado por el departamento de sanidad y desde luego con profesionales y expertos en sanidad las claves estaban en profundizar en una serie de cuestiones en transparencia en democracia en participación en rendición de cuentas en ética

en conformación de equipos es decir dentro de una organización del sistema sanitario público también el estatus del directivo sanitario una serie de cuestiones que son interesantes y que abordadas en el dos mil once

y que volvemos a ponerlas de manifiesto el buen gobierno de la sanidad y de los sistemas de salud planteamientos estratégicos para ello buenas prácticas de gestión los órganos de gobierno en las organizaciones de osakidetza

en las sanidad pública el asesoramiento y la participación de los profesionales en la sanidad pública vasca o la participación ciudadana en el buen gobierno de las políticas públicas de salud son elementos esenciales que consagra que consagraba y que sigue consagrando ese código presentado en la anterior legislatura el documento presentado entendíamos y entendemos

correctas recomendaciones fruto de un análisis exhaustivo y la comparación con otros modelos avanzados además de gestión sanitaria inspiradores o

el informe tenía dos fundamentos establecer recomendaciones de carácter institucional y organizativo que promuevan el buen gobierno y otro la buena gestión fundamentada en la ejemplaridad en la ética en la transparencia en la rendición de cuentas como decía antes la participación

así como por otro lado lo público la calidad y la eficiencia de los servicios públicos bien ahí estamos entendemos como entendíamos cuando presentamos esta iniciativa al principio como interpelación que es una interesante aportación de la legislatura anterior

no tenemos ningún reparo en ese sentido en reconocer aquella buena actuación y queremos retomarla queremos reeditarla como es el planteamiento que hemos hecho en relación con

su actualización independientemente de las fórmulas que haya que implementar en relación con esta cuestión es volvemos a recordar aquella interesante comparecencia

tuvimos la oportunidad de tener en este parlamento en relación con las recomendaciones del consejo asesor sobre el buen gobierno de la sanidad pública vasca

esas cuestiones en el frontispicio a la hora de abordar los problemas la situación

en general y tenerlo desde luego siempre como referente en relación con lo que vamos a hacer que es preservar el sistema público de salud que es lo que

y hacerlo claramente para ello hay que asentarlo sobre fundamentos sólidos sobre bases sólidas y esas recomendaciones ese código se hacían eco de ellas

tenían razón los que decían que no llegó a cerrarse del todo la conformación de esas recomendaciones la conformación de ese código ético que le faltaron iniciativas bueno la legislatura acabó también antes de lo que estaba previsto pero en cualquier caso existía un plan de divulgación bueno hay cuestiones que sí

las recomendaciones el trabajo quedó ahí y además

a los gestores también a los usuarios de la sanidad

que ademés estos días preparando

ver cómo se ha evolucionado es decir desde aquel

estamos en ese camino planteado es decir aquel fue un acierto ahora que lamentablemente hemos

como elemento impulsor de aquel plan osasuna zainduz pues bueno vimos que allá acertábamos porque vuelvo a decir en aquella

las propuestas de resolución fueron planteadas conjuntamente por el partido nacionalista vasco

y en ese sentido se plantearon una serie de recomendaciones que les ruego las consulten de vez en cuando porque son de plena actualidad

es seguir apuntalándolas con algún matiz más con alguna actualización con lo que ha sido el desarrollo de esa sanidad durante todos estos años

las recomendaciones todos ustedes las conocen las han podido leer el consejo asesor

ideológicos yo creo que hicieron un trabajo muy correcto a la hora de reflexionar sobre los órganos colegiados

sobre la transparencia sobre la participación como hemos dicho son una serie de recomendaciones que ahí están y en ese sentido y para concluir esta intervención hemos presentado

una enmienda de transacción el parlamento vasco valora el buen trabajo era lo que nosotros

recomendaciones que recoge el documento elaborado y presentado en dos mil once son importantes para la profundización en principios y valores ligados

basándose en esas recomendaciones y en el código de ética y conducta aprobado por el gobierno vasco al que se hizo referencia también el señor consejero

hemos hablado de él en muchas ocasiones y con la ayuda algo

siga adoptando las medidas de buena gobernanza para seguir incrementando las prácticas de buen gobierno en asistencia sanitaria

sabemos que esto es necesario sabemos por la intensidad del trabajo parlamentario en relación con la salud las políticas sanitarias las políticas asistenciales sabemos que esto es bueno sabemos que está ahí pero sabemos que hay que recordarlo esa implicación

con las decisiones políticas o las decisiones institucionales están ahí y debemos escoltarlas debemos secundarlas y debemos impulsarlas yo también quiero agradecer a la señora roncal su interesante enmienda

interesante también que vamos a debatir en las próximas semanas

ha planteado un interesante debate también que se liga con las prácticas de funcionamiento de la administración y de buen gobierno y en ese sentido agradezco que ese sentido

desde el escaño con su permiso para decir que votaremos a favor de la transaccional que han firmado